sí gracias señora presidenta señores consejeros señora consejera señorías el día dos de mayo usted señora consejera anunciaba en rueda de prensa en la cofradía de pescadores de getaria el día de la feria del pescado

según sus palabras este inicio estaba siendo satisfactorio y confiaba en que las capturas fueran en aumento y que su precio medio se equilibrase en torno a los dos euros además animaba a los consumidores para que adquirieran productos de calidad

en esta ocasión entendiendo que su consumo es beneficioso además de por su calidad

efectos sociales que aporta tanto para la generación de empleo como para el futuro del sector de la pesca usted señora consejera dijo que el objetivo del gobierno es

de productos frescos en este caso la anchoa y reintroducir este pescado en la industria conservera con el fin de que vuelva a ocupar en los mercados

antes de la veda que hemos soportado en estos años anteriores hasta aquí señora consejera todo perfecto y oportuno es lo que le corresponde hacer como responsable del área de pesca del gobierno a los cinco días el señor consejero de salud señor darpón anunció que salud detectaba un alto porcentaje del parásito anisakis en la captura de la anchoa del cantábrico y que como consecuencia de la detección de este alto porcentaje del parásito anisakis

se intensificaba la vigilancia en los mercado de abastos establecimientos de venta y restauración para verificar

principalmente nos decía no comer la ancho en fresco cocinarla por encima de los sesenta grados durante más de diez minutos o congelarla a veinte grados durante veinticuatro horas además de otras medidas de manipulación

alarma una alarma desproporcionada porque se hace de manera precipitada

un señor consejero de salud anuncia

la alarma está garantizada por eso hay que ser muy concreto muy prudente a la hora de informar sobre riesgos para la salud y en este hecho concreto y con relación a un parásito en un alimento

y entendiendo por seguridad alimentaria el conjunto de actuaciones prestaciones y servicios destinados a velar por la inocuidad y salubridad de los productos alimentarios en su producción y transformación consiguiendo con ello saludables para su correcta nutrición nos preguntamos señora consejera qué ha hecho elika en este proceso si ha hecho alguna intervención si además de sacar estos días un informe de como refleja la prensa las alertas y los riesgos que lo ha hecho del año dos mil trece y el año pasado lo hizo del dos mil doce está claro que parece que algo le corresponde hacer

tenemos claro que la obligación de usted y del gobierno y de las administraciones competentes es velar porque los alimentos lleguen al consumidor en condiciones saludables también entendemos que el señor consejero de salud tiene que velar por garantizar la salud de los consumidores pero es la obligación

transparente prudente sobre los riesgos en el consumo de alimentos y lo que es evidente es que ambos dos nos dieron información contradictoria sobre un mismo alimento

desde el partido popular entendemos que esta alarma desproporcionada generada por el anuncio del gobierno vasco ha tenido un gran impacto negativo en los consumidores que lógicamente

decidieron no consumirla e incluso tirarla porque mucha población no tenía conocimiento del anisakis aunque nos parezca mentira mucha población de los consumidores un porcentaje alto no conocía el anisakis

por lo tanto hay que informar de manera prudente no con información de trazo grueso no con información

grueso como decía ha tenido a efectos

donde la anchoa del cantábrico ha pasado de ser un producto estrella a sencillamente no estar

lo que apuntaba como una buena campaña se ha convertido en un mar de dudas para el consumidor y en un problema para los establecimientos de venta y la restauración el gobierno vasco tiene la competencia para gestionar los riesgos

el impacto en la salud pública pero también es importante tener en cuenta otros criterios como pueden ser los sociales

medir las consecuencias además de la gestión del riesgo es importante cómo se comunica entendemos que la comunicación debe ser proporcional prudente transparente completa y concretando a quien va dirigida

de un parásito en un alimento que un alto porcentaje de polen en la atmósfera no es lo mismo no es lo mismo y este anuncio

grueso sin saber qué es alto porcentaje qué es medio porcentaje qué es bajo porcentaje hay que decir que

pedimos que este gobierno trajese a la cámara un proyecto de ley de seguridad alimentaria el gobierno dijo que no el grupo que apoya al gobierno en esta cámara con otros grupos de la cámara

en aquella enmienda de transacción se decía que en el plazo de seis meses se iba a hacer un borrador de un plan de seguridad alimentaria que contenga

plan de control de la cadena alimentaria planes de formación e investigación en seguridad alimentaria plan de coordinación interinstitucional

un borrador de un plan estratégico para la industria y calidad alimentaria

han pasado ampliamente los seis meses nada de este compromiso hemos visto y sí constatamos que la descoordinación es un hecho y seguimos desnortados en la gestión de los riesgos para la salud de los consumidores

y que como se ha visto en el caso que nos ocupa nos evitaría muchos problemas de coordinación de análisis de gestión y comunicación de los riesgos también el gobierno dijo que no señora consejera

a mandar mensajes contradictorios sobre el consumo de la anchoa del cantábrico

y también nos gustaría saber señora consejera cuáles son los motivos por los que a día de hoy no se ha cumplido la enmienda de transacción aprobada en esta cámara en octubre
de dos mil trece nada más muchas gracias eskerrik asko

ni siembra de alarma ni confundir a los ciudadanos que son más inteligentes de lo que usted aquí ha dado a entender ni perjudicar el futuro del sector ha habido coordinación trabajo en equipo rigor

poner por encima de todos los intereses la salud de los ciudadanos y ciudadanas de euskadi desde el gobierno vasco se ha actuado con responsabilidad

población este gobierno trabaja con dos actuaciones muy concretas pero que forman parte de una misma estrategia que es el objetivo por las personas poner a las personas en el centro de nuestras políticas

la salud de las personas y velar por el sector económico de la pesca y de la comercialización en este caso

como usted dice el pasado dos de mayo de dos mil catorce coincidiendo con el antxoa eguna en getaria el departamento

damos a conocer los datos de la costera del verdel y además aportamos los primeros datos

y hablamos también de un precio que se estaba dando en ese momento y que esperábamos que pudiera alcanzarse un techo de dos

usted bien ha recordado el gobierno vasco a través de acciones como esta como la del antxoa eguna en getaria u otras

en toda euskadi pretende poner en valor el producto pesquero no solo el de la anchoa sino todo el producto pesquero y por tanto

marcado desde el inicio de esta legislatura que es el de asumir el compromiso de defender los intereses de los arrantzales de euskadi comprometidos con una pesca responsable y artesanal en esta línea realizamos además un llamamiento al compromiso de los consumidores en el acto de la compra para que priorizaran la compra de la anchoa de euskadi frente a otros productos ya que estamos valorando que era un producto de calidad y un producto de temporada

esas características de pesca artesanal y comprometida con la responsabilidad

el seis de mayo como consecuencia de inspecciones realizadas en distintos alimentos frescos se detecta que en las capturas de anchoa hay un

con eso queremos decir superior al habitual de anisakis en las anchoas tratándose de un parásito relativamente frecuente en los pescados frescos de consumo habitual de forma coordinada absolutamente coordinada con el departamento de salud difundimos una nota de prensa dando a conocer

y siendo esta nota en absoluto alarmista se la puedo leer completa pero voy a

y se decía se recuerda que el anisakis es un contaminante natural y habitual

y que con una preparación y un tratamiento culinario adecuado se evita el riesgo

es decir se puede y se debe preparar en buenas condiciones y con eso se evita el riesgo y decíamos más esta situación no es óbice para que el consumo de pescados siga formando parte de una dieta equilibrada y variada

indicadas por tanto lo único que décimos es recordar las medidas más adecuadas para que ese consumo se realice de forma segura en ningún caso se siembra alarma sino todo lo contrario se aclaran conceptos además el departamento de desarrollo económico

así como de las actuaciones informativas que se están realizando por el gobierno en definitiva las actuaciones y mensajes de los departamentos implicados el de salud y el de desarrollo económico y competitividad

y en ningún caso han perjudicado el futuro de nuestro sector consideramos que la información realizada ha sido para recomendar

al día de una serie de precauciones y posibles complicaciones por la presencia de anisakis en este caso de la anchoa pero también en otros productos frescos

ha influenciado en ningún modo el precio medio ni la venta

realizamos un seguimiento y evolución de las descargas y ventas de anchoa como usted bien conoce y hemos podido comprobar tras un análisis de esa información evidentemente una información en promedio

antes y después de esa nota de prensa la conclusión del análisis realizado es que no es posible distinguir una variación en el precio de venta de la anchoa atribuible

los factores principales como usted bien conoce además son el tamaño del pescado en este caso de la anchoa el destino comercial fresco o conserva el volumen de capturas y son estos los factores que prevalecen sobre cualquier otro factor en este caso

no obstante no cabe duda que la aparición en los medios de comunicación de esta noticia ha podido modificar el destino de consumo

de un consumo en fresco a un consumo en conserva eso no significa que se haya producido ningún tipo de daños sobre la captura aunque todavía no disponemos de datos reales definitivos consideramos que el sector conservero ha absorbido una parte de la bajada del consumo en fresco y ha sido también el responsable de que no haya registrado bajada en el precio de ese sector

el gobierno concluye que actúa de forma correcta y coherente responsable recomendando a la población el consumo de la anchoa por los beneficios que reporta para la salud y a la vez recomendando buenas prácticas para su correcto consumo y el no daño en la salud de todas las personas de euskadi tomando las adecuadas precauciones como le decía los datos y análisis estadísticos muestran que esta noticia no ha tenido influencia negativa alguna en el precio ni en la venta de la anchoa

ambos intereses los de los agentes implicados en la pesca y en la comercialización y sobre todo la salud de los ciudadanos de este país eskerrik asko eskerrik asko

señora consejera me sorprende que persista usted en algo que no es real usted dice el precio de la anchoa no ha variado
mire al día siguiente mercado de bilbao

venta al público en lonja se pagó dos euros no no se pagó dos euros si en venta al público estaba a uno coma noventa y cinco bajó cinco euros el kilo de un día a otro qué pasó

eso ha sido real esos son datos reales

han sido muy afectados usted sabe y mire

no es que lo diga yo lo dijeron los periódicos todos los periódicos los pescadores consideran que ha habido una mala gestión de la información sin motivo

y lejos de corregir el error y reconocer que ha habido un error persisten

usted cree que así genera credibilidad este gobierno no

errores podemos cometer todos y cuanto antes lo reconozca

señora consejera mucha más credibilidad porque en otra ocasión es que con las cosas de comer no se juega eso es algo que nos han repetido desde pequeñitos

ustedes con esto no están siendo rigurosos y serios estamos hablando de una contaminación en un alimento y hay muchos ciudadanos

que hay un porcentaje tolerable de un parásito en un alimento

solamente el porcentaje tolerable que algunos lo entendemos otros no lo entienden

que es así que es así anisakis ha habido toda la vida no entendemos una alarma que nos perjudica

si llevamos dos años con una afección importante afectados de anisakis con un número importante afectados de anisakis por qué se hace este anuncio justo en el inicio de la campaña de la anchoa por qué

programación de comunicación de un alimento eso es una evaluación del riesgo

cómo comunicar a los ciudadanos evitando esto que ha pasado una alarma eso es lo que hay que evitar señora consejera por lo tanto

un error que lo podemos entender pero lejos de corregirlo

es que no generan ninguna confianza animan a mantener la desconfianza a quien ya la tiene por lo tanto señora consejera

esto no es real le he preguntado por qué ha hecho elika

le he preguntado por una iniciativa que se aprobó en esta cámara y que creo que su grupo político grupo que representa al gobierno en esta cámara como el resto de grupos que

hacerlo en seis meses y ahí hablábamos de planes de riesgos hablábamos

señora consejera hablamos de seguridad alimentaria que es muy importante yo creo que lo que se debe hacer es como le decía saber de qué estamos informando a qué población nos dirigimos muy importante a qué población nos dirigimos

no se puede hacer una información de trazo grueso un alto porcentaje pero que es un alto porcentaje es lo que se preguntaba todo el mundo qué es un alto porcentaje en qué parámetros nos movemos qué es un porcentaje tolerable señorías creo que se ha cometido un error y lo mejor que pueden hacer es corregirlo eso sería para mí

máxime cuando hablamos de una contaminación en un alimento eskerrik asko

señora lópez de ocariz porque como con las cosas se comer no se juega precisamente por eso y precisamente porque hay mucha ciudadanía que quizás no conoce los riesgos que se producen como consecuencia de una ingesta de anisakis si uno es alérgico

hay que dar pautas de funcionamiento como se ha hecho en este caso pautas para comer una serie de productos de forma segura que es nuestro principal objetivo la seguridad

en otros años ha habido un importante número de afectados en este caso lo que tratamos de prevenir

siga creciendo y que se produzca un riesgo que puede ser evitable

siguiendo unas pautas de cocinado de ese tipo de alimento para evitar todo tipo de riesgo por tanto alarma

y le voy a dar unos datos porque es que no me sirve al día siguiente le voy a decir primer análisis realizado entre la semana del doce al dieciocho de mayo justo después de la nota el precio medio de la anchoa es de

cinco al once de mayo precio medio de todo lo que se evalúa si tenemos en cuenta la referencia

euros por kilo más datos después de la nota de prensa

aquella en la que entran menos de treinta anchoas por kilo presenta un precio mayor todavía cuatro coma siete euros por kilo que el promedio de otros años dos mil once dos mil trece que era de tres euros por kilo por tanto como le digo la influencia en los precios de la anchoa no está

en el tamaño de la anchoa en el nivel de capturas

bien conoce por tanto vamos a dejarnos de hacer un poco de demagogia en este caso la coordinación ha sido perfecta

elika y el departamento de desarrollo económico y se han tenido en cuenta ambas cosas la salud de las personas y el aspecto económico de la pesca y se ha observado

y los precios de la anchoa han continuado prácticamente en los mismo niveles dependiendo del tamaño evidentemente y no de la nota o no nota

la salud de las personas y por tanto en este caso y en cualquier otro trabajaremos porque todas esas pautas de funcionamiento de comercialización y de consumo sean las más adecuadas así se ha hecho sin sembrar ningún tipo de alarma y aclarando perfectamente a quién iba a dirigido no tenga usted ninguna duda de que esto se seguirá haciendo así compaginando ambas actuaciones la salud de las personas y el desarrollo económico en este caso del sector de la pesca

sin duda una de las responsabilidades del departamento de salud es garantizar la seguridad alimentaria

en euskadi hemos tenido además experiencias de gestión de crisis de seguridad alimentaria especialmente el caso de las vacas locas que revelaron la necesidad de ofrecer toda la información

tuvo un impacto más que notorio en toda españa el hecho de que se emitiera la nota advirtiendo una presencia del parásito superior al habitual tuvo un eco inmediato en los medios digitales alcanzó a los medios audiovisuales y prensa escrita tanto de ámbito nacional como de ámbito

de otros gobiernos de comunidades con flota de bajura que no constataba en el mismo hecho en los días siguientes quienes acudíamos a las pescaderías tuvimos conocimiento directo

no se vendía anchoa soy testigo no se vendía anchoa y también tuvimos constancia de las quejas de los agentes del sector

en navarra y en las comunidades cantábricas una semana después de esa nota el consejero de salud señalaba en una emisora que su alarma había sido eficaz

sino la repercusión de la forma de informar en una campaña de la anchoa que se había apoyado y promocionado unos días antes por parte de su consejería por eso le preguntábamos señora consejera si entendía usted que se dio la información adecuada y si esta había tenido un efecto en la comercialización de la anchoa nos ha dicho que sí que se actuó de forma correcta y responsable

si ocurriera lo mismo eskerrik asko

he detallado algunos aspectos pero sí quiero reiterar que la actuación ha sido perfectamente coordinada medida y bien trabajada entre los dos departamentos

por encima de todo como lo he dicho en mi anterior intervención la salud de las personas

hay que darla en el momento adecuado porque sabemos perfectamente que no afectaba solamente a nuestro comunidad sino a todos aquellos ámbitos en los que

pescada en el cantábrico y no solamente en euskadi sino toda la desembarcada en puertos de euskadi aunque no se hubiera pescado en nuestras aguas había barcos de otro tipo de flotas de flotas quizá de cantabria que venían a desembarcar

en nuestros puertos que también tenían el mismo problema es obligación de un gobierno tomar esas medidas y desde luego lo haríamos

de la misma forma que lo hemos hecho porque es obligación nuestra poner por encima de todo la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas

decir por una parte que es bueno que es adecuado el consumo del pescado fresco el consumo de la anchoa en nuestro caso pero hacerlo de una forma adecuada simplemente alertar de que puede haber problemas y no para todas las personas pero para las personas alérgicas y que por supuesto

ha sido el objetivo principal y desde luego continúa siéndolo

que usted acudió a una pescadería y había problemas yo no digo que en unos momentos puntuales no haya habido como medida en su conjunto el departamento ha trabajado codo con codo con el sector de la pesca que es el que nos corresponde como responsabilidad y le he dado los datos correspondientes

por esta situación por tanto desde el punto de vista del sector económico desde luego no hemos causado ningún tipo de alarma innecesaria y creo que hemos prevenido
más problemas de los que se podían haber producido desde el punto de vista de salud eskerrik asko tapia

consejera pocas veces una información sectorial del gobierno vasco ha tenido un impacto informativo tan alto

en todo tipo de medios en todas las líneas editoriales de todos los ámbitos geográficos y todos interpretaron igualmente esa nota del departamento como una alarma

leemos y le explico el diario montañés cantabria no detectado niveles de anisakis en anchoas superiores a los años anteriores al contrario que el gobierno vasco deia diez de mayo la noticia ha sido recibida con preocupación para los arrantzales de la flota de bajura

solo nos faltaba eso el revuelo sobre anisakis nos va a perjudicar navarra

el precio de este pescado se ha reducido a más de la mitad el departamento de salud del ejecutivo foral no ha recibido ningún comunicado del gobierno vasco ni de la agencia española de consumos seguridad y nutrición

la voz de galicia el trece de mayo cae el consumo de anchoa tras alertar el país vasco de anisakis diario montañés de quince de mayo las autoridades sanitarias tranquilizan al consumidor anisakis ha habido siempre

afecte de manera importante a los consumidores con todo esto lo menos que cabe es recordar que la comunicación no solamente fue incorrecta sino que provocó un perjuicio que se pudo evitar

y casi se llevan por delante la campaña de la anchoa y el sector que de ella depende el daño está hecho y lamento porque me temo que van a persistir

eskerrik asko presidente andrea nosotros debemos ser persistentes pero

la nota informativa pretende eso informar y es una nota informativa que en un determinado momento se tome con preocupación evidente pero desde luego no voy a insistir en leer toda la nota pero desde luego lo que se dice es se recomienda mantener una serie de precauciones

complicaciones y habla de cómo se debe preparar y consumir el pescado el respeto a las opciones de preparado culinario y se habla

sigue siendo un alimento desde luego importante en nuestra dieta y que con un tratamiento culinario adecuado no provoca problemas por tanto la alarma yo no la veo por ningún sitio solamente hay una nota informativa de carácter de salud

que otras comunidades no la hayan detectado no quiere decir que aquí no la hayamos detectado y hayamos tomado las medidas oportunas nosotros somos responsables de nuestras actuaciones y desde luego

hemos hecho prevalecer la salud sobre cualquier otro elemento e insisto los datos de los que consta el departamento trabajando con el sector indican que en su conjunto la campaña no se ha visto afectada y además ha sido una campaña

que las de los últimos años ha sido una campaña exitosa sí es cierto que en un determinado momento pudo haber algo de preocupación pero en este caso después

gauzak ez dira konfrontazio bidetik konpontzen porque le recuerdo señora arrondo que los niños y niñas del municipio de sopuerta tienen plenamente garantizado el derecho a la educación

así como de los índices de natalidad y lo está haciendo pero hoy por hoy no me puede usted decir que no existe una oferta educativa adecuada

otra cosa es que el ayuntamiento quiera y pueda desbloquear la situación con el obispado para liberar las instalaciones existentes de las actuales condiciones derivadas

el departamento está dispuesto a apoyar dicha iniciativa y realizar los trámites necesarios para ampliar la oferta educativa pública del municipio de sopuerta también a la educación primaria

irakurriko ditut la negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos

presupuestaria obligatoriedad buena fe negocial publicidad y transparencia gero gehitzen du

en caso de alteración sustancial de las circunstancias económicas y permite que los órganos de gobierno de las administraciones públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de pactos y acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria

en primer lugar me gustaría apuntar que es la primera vez que le veo a usted o a su grupo interesarse por el actual

sea para la motivación o no incluido su modelo de retribución de méritos y objetivos respecto a las convocatorias del mismo efectuadas en el año dos mil once y dado que veo que me pregunta por lo que ha oído

y me parece muy bien la cantinela del empleo pero explíqueme luego cuando vuelva en qué afecta

al empleo porque no le acabo de entender igual con una explicación suya lo comprendo mejor bien

y las centrales sindicales concretamente satse comisiones

sobre la regulación de requisitos formas plazo de solicitud procedimiento de evaluación y asignación del nivel en la convocatoria ordinaria

profesionales de osakidetza correspondiente al ejercicio dos mil once

una convocatoria extraordinaria le voy a resaltar de nuevo la fecha veintiuno de diciembre del dos mil once y le voy a resaltar también

la ausencia de mayoría sindical en el acuerdo posteriormente el veintitrés de diciembre del dos mil once exactamente cuarenta y ocho horas después

este parlamento aprobó la ley seis barra dos mil once de presupuesto generales de la comunidad autónoma de euskadi para el ejercicio dos mil doce y en su artículo diecinueve punto once establecía lo siguiente

los acuerdos convenios o pactos de los empleados públicos de la administración de la comunidad autónoma los organismos autónomos consorcios del sector público

quedarán suspendidos en su aplicación se lo voy a repetir otra vez quedarán

deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al presente artículo yo no estaba por aquí es decir

contemplaba esta cláusula se suscribe en el seno de la mesa sectorial un pacto incoherente

difícilmente ejecutable posteriormente

el veintinueve de diciembre el veintinueve de diciembre fíjese usted la diferencia de tiempo seis días después se regulan los requisitos solicitudes procedimiento de evaluación de asignación del nivel de desarrollo profesional para las profesionales comprendidos en su ámbito de aplicación y también voy a resaltar para que lo apunte usted

una resolución del veintinueve de diciembre hasta el diecisiete de abril del dos mil doce

once se acuerdo un pacto con efectos retributivos para el dos mil doce

el veintitrés de diciembre el parlamento aprueba los presupuestos generales que incluyen un texto no admitiendo incrementos retributivos el treinta de diciembre dichos presupuestos se publican

se publica la resolución de la convocatoria resultante del pacto en el boletín

el veintiuno de diciembre se firma un pacto que el veintitrés de diciembre no se puede cumplir

que materializa dicho pacto el veintiuno de diciembre pero no se pública hasta el

del año siguiente en fin el veintiuno de diciembre se dice sí a lo que el veintitrés de diciembre es que no y lo que es que no se ratifica el veintinueve de diciembre

del año siguiente es un poco difícil de entender igual por esto

se publica la ley orgánica dos barra dos mil doce de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que establece nuevas exigencias en materia

que seguro usted y los demás parlamentarios conocemos y mientras tanto todos y todas incluida la representación sindical

lo que es una convocatoria de esta naturaleza solicitudes presentación de documentación etcétera

nadie dice nada y la convocatoria de los procedimientos consecuencia de la misma sigue en su curso

también sabemos que en un estado de derecho las normas y las leyes no va a quedar más remedio que cumplirlas

toda esta situación descrita que supongo que usted señora ubera conoce y de la que me he limitado de describir los hechos más relevantes es la razón que ha llevado no a este consejero

a adoptar las medidas de suspensión de las convocatorios ordinaria

por la que usted se ha interesado exclusivamente

por otro lado resulta también obvio que desde el veintiuno de diciembre del dos mil once

hasta el diecisiete de diciembre del dos mil doce fecha de toma de posesión del actual gobierno

y definitivamente la convocatoria una explicación puede ser la falta de tiempo material y otra puede ser que tampoco era posible resolverla legalmente horrela

realiza un análisis de la situación descrita y con cierto asombro el análisis jurídico concluye que dicho pacto y en consecuencia la convocatoria legalmente no pueden ejecutarse

se ha enterado usted de este problema el uno de mayo cuando ha preguntado

esta convocatoria estaba en suspenso sin resolver era público

diecisiete meses y medio no se ha ocultado esperaba usted una solución diferente a la que se ha dado o hasta ahora no conocía el problema generado

la convocatoria no se podía resolver como estaba prevista y era de sobra conocido por ello desde el ejercicio de nuestra responsabilidad

del análisis efectuado y seguramente corriendo a usted y de la decisión que se iba a adoptar se les informó el veintinueve de abril y se les informó de lo que ya sabían para con posterioridad como ya bien han dicho el ocho de mayo el director general de osakidetza

dejando en suspenso las convocatorias pero no ha corrido el director general porque se lo contaran a usted lo ha hecho después de informar a la mesa sectorial

se han generado expectativas de mejora económica en los profesionales porque creemos en la negociación colectiva pero la negociación colectiva estará para cumplirla

hartu dugu y le agradeceré que como hoy no toca no me hable usted de la creación de empleo

que vale para un roto y para un descosido balio dute komeni zaigunerako

la falta de programa sanitario no sabe usted qué tendría que hacer con osakidetza entonces estamos todo el día con el recorte

como no tiene programa sanitario me pregunta cada vez que nosotros nos movemos en algo o por lo que sale en el periódico o por lo que nos movemos

aportaciones este es un ejemplo claro se comunica a la mesa sectorial

nunca ha preguntado ni qué habría que hacer con el desarrollo profesional ni si está bien o mal pregunta

programa señora ubera programa no todo es el recorte ni el tren

es el argumento que vale para todo como ya le he dicho la decisión adoptada ha sido difícil porque si sabe usted quién puso

pues fue el partido nacionalista vasco el partido nacionalista vasco dotó al sistema sanitario de euskadi de desarrollo

ese fue el recorte del que les dotó y permítame reiterarme en la decisión ha habido responsabilidad y sensibilidad porque no le he oído a usted decir cómo podríamos pagar

ya me gustaría le emplazo a usted llevame a la comisión de salud

y debata conmigo a ver como podemos pagar con esa ley que usted ha analizado también responsabilizad en analizar la situación correctamente desde el punto de vista legal

para tener seguridad jurídica con respeto a los trabajadores

hemos tomado la única decisión posible y se les ha informado como le decía la reflexión el análisis y las conclusiones

han empleado esfuerzo en presentar sus méritos y la documentación que los acredita

no solo hay que respetarlo sino validarlo así mediante el procedimiento que hemos empleado se mantiene la validez de las actuaciones realizadas en la convocatoria

hasta que pueda acordarse el levantamiento de la suspensión conforme se establezca en la ley de presupuestos de la comunidad autónoma de euskadi que es la clave

la retribuciones nos veremos en los presupuestos del año que viene señora ubera
igual entonces ya no es un problema y a usted se le ha olvidado eskerrik asko eskerrik asko

zurea da hitza eskerrik asko presidente anderea bueno señor consejero vamos con los famosos tulipanes parece que se ordenó
retirar de la subdirección de salud pública y direcciones de álava

por tulipanes blancos y queremos saber desde el grupo popular qué criterios de salud le han llevado a tomar esa

pero tengo que confesarle en primer lugar que es falso que este consejero haya ordenado retirar tulipanes de color amarillo para sustituirlos por otros de color blanco y realizar una ikurriña floral que no me hubiera parecido mal pero

no responde a la verdad señora garrido pero dado el juego que este asunto les ha dado y el interés que percibo que personalmente muestra en el asunto

y privadas que he desempeñado he intentado velar por el buen estado y el mantenimiento de los edificios que estaban bajo mi responsabilidad

en orden limpias bien señalizadas en buen estado de mantenimiento

tener el edificio en buenas condiciones incluidos los jardines lo demás

novelado en relación con las indicaciones que da este consejero zaude lasai garrido andrea lasai asko egon zaitezke izan ere

pues la verdad señor consejero tengo que decirle como usted bien sabe un hecho absolutamente

la verdad es que miré el calendario por si habíamos retrocedido

el día de los inocentes el veintiocho de diciembre y por otra parte señor consejero no me extraña

este episodio más propio de una parodia de martes y trece o de vaya semanita lo que usted quiera y nunca desde luego desde el grupo popular hubiéramos pensado que los tulipanes

pudiera representar un riesgo para la salud de los vascos

tulipanes rojos y amarillos pudiera llevar a ser tan ofensiva a la visión de algunos mortales mejor dicho que esta combinación de los colores rojos

que llevara a tomar la decisión de retirar los pobres tulipanes

de nada y sustituirlos por unos blancos yo no sé señor consejero si la coexistencia de estos dos colores en los múltiples paisajes de nuestro entorno le puede llevar incluso a decretar

rojos y amarillos y que pueda representar un peligro real a la salud y a la mirada

más bien tiene que ver con la obsesión de algunos y resulta realmente chocante señor consejero que con

como puede ser velar por la salud de todos los vascos de todas las vascas se dedique a vigilar los adornos

le ha caído encima que es ni más ni menos que velar por la salud de todos nosotros

a realizar una gestión magnifica eso está por ver obviamente está por ver llevamos un año de legislatura podrá realizar una gestión magnifica en la salud y emprender políticas muy buenas en materia de salud que mejoren sustancialmente en

los vascos pero usted tiene el riesgo de que se le recuerde por el llamado episodio de los

y señor consejero le aconsejo que desde luego no se meta en más jardines en los tres años que le quedan de legislatura que la sanidad con o sin tulipanes sean rojos o amarillos o del color que sean tiene muchos retos y desafíos

y que no se detenga en la decoración floral por muy dañina que le resulte a la vista

lo primero señora garrido a mí no me ha caído nada

muy honrado de la responsabilidad que ostento y de verdad que no creo que me haya caído nada dado mi profesión anterior yo distingo muy bien entre alergia

y alergia es los pacientes creo que tenemos problemas más relevantes que tratar usted el resto de las cámaras y sin ninguna duda yo

rojo y amarillo no tengo ningún problema en contestarle no son mis colores no creo que esto le sorprenda ni a usted ni a nadie por otro lado

irizpideei buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza sí gracias señora presidenta señor consejero el siete de mayo usted anunció

que su departamento había detectado un alto porcentaje del parásito anisakis en la captura de la anchoa del cantábrico

anunció también unas medidas unas pautas de su consumo y

la anchoa quisiéramos saber señor consejero qué criterios de calidad y seguridad

anuncio teniendo en cuenta los perjuicios o la alerta que ha supuesto para los consumidores y los perjuicios que

habla usted en la intervención anterior de que ha habido toda la vida cosas así mire la descripción de la alergia por anisakis se produjo en vitoria en el hospital santiago apóstol

no tiene más de veinte años luego cuando décimos que ha habido toda la vida permítame darle a usted el beneficio de la duda

y en particular el del departamento de salud por la salud las medidas que hemos dictado están

que no hicimos nosotros y que son de obligado cumplimiento para la restauración en centros de restauración colectiva y restaurantes y nosotros lo único que hemos hecho es constatar que hay un alto nivel mayor que el de los años precedentes y decir que lo que es ley para la restauración colectiva tenga la ciudadanía cuidado el anisakis plantea un riesgo para la salud humana en dos sentido a pocas horas de su ingesta genera cuadros de dolor abdominal náuseas y vómitos

grave en el caso de la alerta por la que se interesa el siete de mayo apunte usted el área de salud y consumo del ayuntamiento de bilbao comunicó al departamento de salud del gobierno vasco la presencia de un nivel de parasitación muy elevado en todas las partidas que entraban de anchoa en mercabilbao alertando

un riesgo para la salud pública y la persona es la misma que revisa las partidas desde hace mucho tiempo concretamente

no un político ante esta situación la dirección de salud pública decidió inspeccionar y monitorizar el resto de partidas de anchoas que se descargaban para el consumo fresco en nuestros mercados

la alta infestación por anisakis por ello y ante la evidencia de que la anchoa es en nuestra cultura gastronómica el único pescado que se suele comer

se decidió hacer públicas unas recomendaciones para como usted ha dicho en la intervención anterior

que no sabe que la anchoa puede tener anisakis pues sí para que sepan y tomen sus propias decisiones

porque es de sobra conocida y francamente respetuosa eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna lópez de ocariz andrea zurea da hitza

y es velar por la salud de los ciudadanos y que para los ciudadanos la salud es el bien más preciado por eso por eso mismo cuando se informa sobre riesgos para la salud es prioritario hacerlo de manera prudente de manera de manera concreta de manera transparente proporcionada y teniendo en cuenta también otros criterios como le decía anteriormente sociales

riesgo y además se debe revisar en un plazo razonable porque usted anunció esto el siete de mayo

no ha anunciado usted porcentajes posteriores cómo que los pida yo pero si es usted el responsable usted me dice que está cumpliendo la ley y a la semana siguiente qué anuncia usted en prensa no hay ningún problema para comer la anchoa oiga señor consejero

en radio vitoria en una entrevista no hay ningún problema para comerla hay problema o no hay problema para una persona que oye por primera vez que en el pescado hay un parásito desde luego usted no es que la ha confundido es que

en muchísimo tiempo mire señor consejero no se entiende por qué anuncia usted este alto porcentaje justo

que tienen anisakis todo el año muchas variedades de pescado que tiene

no han hecho ustedes campañas informativas tranquilas

claras con el ánimo de informar no de alarmar

ha tenido o no ha tenido ha tenido porcentaje tolerable alto medio bajo no sabemos

de qué va a depender el porcentaje y el anuncio que usted haga señor consejero se equivocó en el fondo

en los dos últimos años ha habido más un aumento un repunte de los afectados por anisakis por qué usted no ha hecho este llamamiento en otro periodo no justo esperar al inicio de la campaña de la anchoa por qué

no diferencia entre población sensible y población

hay población a la que no le afecta el anisakis no

puede que no puede que no señor consejero no no se haga el estupendo lo ha hecho mal se ha equivocado

lópez de ocariz le está tocando hacer el papelón de defender el criterio económico sobre el de la salud no es

de las personas me ha sorprendido que usted diga que es imprudente recordar las medidas que están en el real decreto mil cuatrocientos veinte de dos mil seis que es

y vuelve usted a lo mismo vuelve usted a lo mismo no es un problema de porcentajes

es un problema de riesgo simplemente y además en nuestra cultura no hay riesgo alto con el verdel con la merluza con el bonito porque lo comemos cocinado ahí está la diferencia entonces lo hemos anunciado

cuando la ancho la gente no lo relaciona con ese anisakis y cuando hay

si usted considera que el gobierno debe ocultar información al consumidor sobre riesgos evitables para la salud si considera que hubiese sido mejor no informar de la presencia de anisakis si considera mejor que no se hubieran recordado unas medidas sencillas que están en la legislación para poder

este consejero no lo comparte en absoluto eskerrik asko darpón jauan